mahaiburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on denoi la teoría de la evolución explica
que tras una exitosa mutación esta se transmite a las siguientes generaciones y se fija

sobrevivir a otras especies lo que no se había descrito nunca es una mutación transmitida asexualmente en este caso una mutación transmitida por pnl va el señor rajoy y dice que se le ha ocurrido una nueva mutación ignorar a la administración lo cual está muy bien y automáticamente por arte de birlibirloque y sin posibilidad de que otras administraciones evolucionen como les pueda interesar

esta proposición no de ley la teoría de la evolución que lo mismo sirve para seres vivos que para órganos de la administración no lo duden ha quedado hecho añicos se ha transformado en la teoría de la mimesis o de la imitación

aclaremos resulta que el tres de febrero del dos mil catorce el gobierno español publica un decreto y fusiona el organismo

y crea una nueva agencia que junta todo tres días después a la velocidad de la luz el partido popular presenta una pnl en la que solicita

aquí en el país vasco entre kontsumobide y elika es una mimesis porque sí imitación por imitación suposición de que el gobierno vasco y el gobierno español deben ser el mismo miméticos convicción de lo que decía rajoy no solo es bueno para españa es que es bueno para el mundo empecemos por el principio señora lópez de ocariz

se crea el veintiuno de enero del dos mil uno diez años antes de lo que usted ha dicho eta data horrek badu bere garrantzia izan ere

está claro que efectivamente en última instancia su misión es preservar la salud de las personas consumidoras pero el concepto moderno de seguridad alimentaria abarca aspectos como la suficiencia alimentaria el medio ambiente

aspectos todos ellos que como usted comprenderá no encajan para nada en el papel de kontsumobide

zeregina por otra parte kontsumobide si bien se creo por ley en dos mil siete

es contribuir a mejorar el equilibrio la transparencia la armonía en las relaciones entre estas y los mercados fomentar la responsabilidad de todos los agentes implicados y resolver conflictos

kontsumobide interviene siempre que haya o pueda haber relación entre personas y mercados

científicos y expertos en comités que asesoran permanentemente sobre riesgos alimentarios prevén riesgos

siendo en última instancia y ante un problema concreto kontsumobide la que interviene para retirar determinadas partidas alimentarias alertadas por elika o por cualquier agencia alimentaria europea que las hay y a cascoporro y casi todas ellas separadas de sus respectivos kontsumobides baina

el solo hecho de recorrer su consejo explica la amplitud del trabajo de elika

que tienen una cantidad enorme de competencias en la materia se coordina con salud pública porque de riesgos para la salud estamos hablando y se coordina con consumo porque también hablamos de alertas de consumo pero no de fraudes de alertas de seguridad son organizaciones que tienen que funcionar coordinadamente

es coordinación con fusión o indiferenciación del trabajo estamos hablando de organizaciones diferentes con operativas diferentes y con objetivos claramente diferenciados

y determinó que deberían seguir como estaban el gobierno vasco anterior al que usted

de una manera muy importante en la organización del departamento de agricultura

organizativos y de estructuras concluyó que elika estaba bien cómo

a qué viene ahora esta propuesta a decirnos que ustedes se equivocaron en el anterior gobierno y que ahora rajoy ha hecho bien corrigiéndoles y que al tener la verdad absoluta aquí tenemos que hacer lo mismo contra el simétrico modelo de upyd ustedes defienden la simetría madrid decide el resto copia no me preocupa la evolución de la administración central lo preocupante es su intento de transmitir sus cambios a los demás por pura mimesis cuando no por decretos o aplicación torticera de leyes

en cualquier caso hay que reconocer que este sistema es más democrático usted lo trae lo debatimos y se vota quisiera aquí agradecer

la comprensión y la colaboración del grupo socialista a la hora de hacer esta transacción que no es tan inútil como usted dice tiene bastante más sentido de lo que usted está trasladando a este pleno

a menos que creáis en vosotros mismos nadie lo hará la fusión española o la fisión vasca

consiste en nuestra capacidad para equivocarnos y en saber corregirnos
y en creer en nosotros para hacerlo nosotros muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta el grupo popular propone acertadamente que elika y kontsumobide se integren única entidad y a partir de ahí propone esta iniciativa para que instemos al gobierno vasco a que adopte las medidas y actuaciones que sean necesarias para que

para la seguridad alimentaria se integren en una única entidad y tal y como dice en la justificación de su iniciativa

y aunque cada uno de ellos tiene áreas de actuación especificas lo cierto es que los dos disponen de líneas de trabajo de carácter administrativo analítico y de investigación

rentabilizar mejor el uso de los recursos públicos estamos absolutamente de acuerdo con la iniciativa planteada por el grupo popular y por lo tanto votaremos

y misión de elika efectivamente no son exactamente los mismos que kontsumobide no deja de ser en nuestra opinión una pata más que podría estar perfectamente integrada en kontsumobide el partido popular lo que hace seguidismo de madrid se ha dicho y efectivamente yo tenía apuntado aquí decir tal cosa que el partido popular hace

del gobierno de españa pero es que es un seguidismo acertado es decir por una cosa bien que hace el gobierno de españa no está mal que nosotros la observemos

de traer esta iniciativa en este caso para aplicarla en euskadi es un seguidismo por lo tanto acertado

bien que el gobierno de españa hace no está mal que nosotros la observemos y tratemos

es una gota en el océano pero es una medida que nosotros

acertada qué es lo que propone el grupo socialista efectivamente un informe sobre la situación de duplicidades ineficiencias

que se generan en este caso en el ámbito del departamento de desarrollo económico y competitividad y que pueden resolverse con otra estrategia de racionalización y redimensionamiento de las distintas fundaciones y empresas participas proponiendo las soluciones y otra vez

que aplicarse otra vez en el futuro más o menos inmediato o lejano es decir otra vez nuevos informes nuevas estrategias

a aplicar que sean necesarias para llevarlas a cabo o aplicarlas no ahora ya veremos quizás más adelante esto es lo que propone el grupo y qué es lo que propone el grupo nacionalistas vascos optimizar la coordinación entre elika y kontsumobide en aquellos asuntos de interés común y actuación

a reconocer que ambos organismos están relacionados y además que no están bien coordinados es decir el partido nacionalista vasco y el partido socialista en euskadi con sus enmiendas vienen a reconocer que este es un asunto que debe contextualizarse en lo que es la estrategia

y redimensionamiento es decir no han dicho o no lo han plasmado así en sus enmiendas que estos organismos deben mantenerse así sino que debe estudiarse dentro de esta estrategia de redimensionamiento y racionalización

la enmienda inicial planteada por el grupo nacionalistas vascos llegamos a la conclusión de que está claro que al partido nacionalista vasco le cuesta y mucho abandonar su política de chiringuitos hasta el punto de que para justificar los propios pretende que el gobierno de españa también mantenga los suyos una cosa tremenda como aquí deben mantenerse los chiringuitos para colocar a sus amigos

que no aplique ninguna estrategia de racionalización o redimensionamiento sino que mantenga sus propios chiringuitos para justificar los propios y los socialistas en su línea de pedir estudios con tanto estudio se van a convertir en unos lumbreras es cierto pero seguiremos padeciendo un sector público

lo cierto es que ya el punto anterior que hemos debatido el pasado del grupo socialista cuando estuvo en el gobierno las propuestas que habitualmente plantea

básicamente son su dejadez y su falta de valentía para haber abordado la cuestión cuando pudieron

de este modo una mejor coordinación estrategias para más adelante pero mantengamos aquí también los chiringuitos por si acaso nos toca algo que es lo que viene a decir el grupo socialista en conclusión lo del pp es una gota de agua en el océano pero menos es nada y aunque no va a salir nosotros la apoyamos efectivamente la transaccional firmada por ambos grupos

para que nada cambie conformado por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi no aporta nada como decía

y como ha quedado de manifiesto en un punto anterior digamos que esta transaccional otro timo monumental de los habituales que gestan acuerdan y pactan el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi nuevos informes nuevos estudios para no hacer nada para dejar todo como está para ver si nos toca algo aquí o allá

vaya usted a saber dónde votaremos por lo tanto a favor

señora corcuera no me sorprende que le sorprenda

del parlamento vasco con las decisiones que toma el gobierno de españa del partido popular porque desde luego la coherencia para ustedes no es una prioridad eso está demostrado en esta cámara y en tantos sitios por lo tanto no me sorprende

es sorprendente como tanto el partido

han omitido cualquier referencia a cómo se hace este tratamiento en la unión europea

a la unión europea me sorprende que no haya hecho ninguna referencia

europea la estructura administrativa que vela por los intereses de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito a la seguridad alimentaria como en el del consumo

por lo tanto según sus argumentos la unión europea menoscaba los intereses de los consumidores porque si el gobierno de españa al haber unificado o puesto en un mismo organismo

y la agencia española de seguridad alimentaria

la unión europea también menoscaba los intereses de los consumidores esto no es algo que se le ocurre al gobierno de españa porque de repente

a alguien es coherente tiene coherencia y además ustedes

en el dos mil once aprueban una ley de simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa la ley que se llamaba de economía sostenible

ningún organismo ni ente ninguno

léase la ley a ver qué exceptúa esa ley

toca todas las áreas de la administración no hay un solo organismo que se exceptúe por lo tanto

ya entiendo que usted tiene que tratar de argumentar su postura pero es que se cae por todos los sitios

estoy segurísima que esta integración que proponemos se va a hacer

no sé si lo hará este gobierno pero se va a hacer porque señorías como vulgarmente se dice técnicamente esta integración es de libro efectivamente falta la voluntad política

pero técnicamente es de libro desde la unión europea pasando por el gobierno de españa y otros gobiernos de estados miembros y otros no todos pero otros también lo tienen por lo tanto técnicamente de libro políticamente no porque mire

es una mera declaración de intención sin plazos sin compromiso alguno para el gobierno está hecha para salvar este momento nada más exclusivamente para salvar este momento ni siquiera traslada al seno de la ponencia para el estudio de la revisión del entramado institucional vasco la integración de estos dos organismos

qué menos que haber llevado a esa ponencia hacer una remisión un acuerdo una enmienda de esta cámara que vaya a la ponencia y digan oiga estudien a ver si esto

porque no tienen voluntad política pero si es que es así mire yo creo que

lo que justifica esta enmienda es que ustedes están más atentos a la música que a la letra

porque decía la señora mendia los socialistas hemos hecho los socialistas hemos hecho los socialistas hemos hecho así hasta seis veces qué han hecho los socialistas tanto han hecho que se les ha perdido en el camino en el tránsito a la oposición

pero dónde está lo que han hecho o usted que nos está contando aquí o entonces no es creíble lo que usted ha dicho aquí no es creíble claro que decía es muy importante la secuencia

es complicado entender su secuencia pero para definirlo así gráficamente

de manera que estamos siempre en la música y no llegamos a la letra esa es la cuestión

gracias presidenta señora lópez de ocáriz que no es el día de la música que es el día internacional del teatro

y está usted teatralizando es que en cuanto uno no está de acuerdo con usted vamos

que no hay quien la soporte porque mire claro no es verdad es verdad

vamos a ver yo es que no acabo de ver de dónde se ha sacado usted la necesidad de que en euskadi hay que fusionar la fundación elika

consejeros ni consejeras lo planteó ahora en el documento de estrategia y redimensionamiento del sector público tampoco

lo ha hecho en madrid y usted a copiar y es que le da lo mismo euskadi que pernambuco y si esto

una fundación para la seguridad alimentaria pues igual te lo tratarán en pernambuco

es que no está siendo usted seria con estos temas y me parece que siguen ustedes dando

entonces le enfada que los socialistas hayamos pactado con el partido nacionalista vasco una enmienda que da salida y que además es coherente como usted dice coherente con lo que se está tratando y se va a tratar en la ponencia de la próxima semana

en euskadi si ese documento ese informe contiene

del sector público vasco la contiene señor maneiro usted dice los socialistas por qué tanto informe porque hombre cuando pedimos informe luego nos lo leemos sabe usted que hay dos uno de ciento cuarenta páginas y otro de doscientos sesenta y dos sino los tengo ahí se los paso

en esta enmienda para hablar del tema del redimensionamiento del sector público porque lo hemos hecho así la anterior legislatura

y que no acabó con ninguna conclusión con ninguna conclusión los que fueron miembros de aquella ponencia lo pueden decir por lo tanto seamos serios nosotros pedimos que se dé una solución y además décimos los socialistas en la legislatura pasada y lo tenemos también en el programa electoral para todos aquellos que les encanta leerse el programa electoral del partido socialista de euskadi pues viene en el programa bien claro cómo

no de consumo señora lópez de ocáriz de salud y lo mismo hablamos de salud alimentaria que de salud medioambiental no que no le gusta pues yo que culpa tengo que el señor rajoy no esté de acuerdo con los socialistas vascos

porque están ustedes basando esas fusiones y esa racionalización de la administración pública en puros recortes en puros recortes y además en recortes de políticas sociales no están por la mejora de la administración

no es verdad y usted lo sabe y la ley de economía sostenible que tanto palo dio además precisamente

en concreto esa ley de economía sostenible usted lo que tiene que tener en cuenta es que efectivamente contemplaba toda la administración

y la agencia de seguridad alimentaria en especial estos dos y proponía la fusión no y usted lo sabe

no es de recibo y usted no pretende hoy que reorganicemos el sector público en euskadi fusionando kontsumobide y la fundación elika

no está por esa labor se lo han mandado los jefes y usted tiene que hacer el papelón
pues bienvenida al día internacional del teatro señora lópez de ocariz nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

en cualquier caso mire señor maneiro usted aprovecha cualquier tema

a mí se me ocurren un montón de adjetivos para calificarle no lo voy a hacer está usted cayendo en el macarrismo político de verdad se lo digo duele la utilización torticera de la semántica que hace en cualquier ámbito en el que trabaja

la enmienda que nosotros presentamos en ningún caso se trataba de mantener chiringuitos en madrid que es algo que a mí

a lo mejor era porque nos preocupa por una vez somos solidarios la seguridad alimentaria de los españoles

yo vengo a hablar de eiika y de kontsumobide y de su posible fusión

por cierto existe la autoridad europea de seguridad alimentaria y el

existen son dos ámbitos distintos vaya usted a alemania o vaya al reino unido y vea como está organizado el sistema y no es un argumento para justificar nada simplemente vaya yo estoy defendiendo mi capacidad nuestra capacidad de organizarnos como entendamos más oportuno

ni de hacer ningún timo a nadie porque lo que

para debatir el sistema organizativo es una pnl fotocopiadora viene

por la misma regla de tres que usted ha mantenido señor maneiro y usted señora lópez de ocariz

la ertzaintza también vigila la seguridad de los ciudadanos

pues vamos a meternos en kontsumobide qué le parece y el departamento de salud también por el argumento que usted ha utilizado podrían estar en kontsumobide gordo gordo

mire lo que están intentando es lograr una uniformidad total empiezan por la imitación

para terminar el ministro cañete y luego el diputado general de álava diciendo que no hace falta euskalmet que ya tenemos la agencia de meteorología española y que quitemos la nuestra

que quiten chiringuitos que fusionen la guardia civil y la policía nacional que esos sí que hacen prácticamente lo mismo e incluso muchas veces se entorpecen

pero yo no se lo voy a proponer aquí es una cosa que tienen que decidir ustedes en el ámbito que tengan que decidir es decir

no vamos a decirle al gobierno español cómo organizar su administración ellos sabrán pero que no nos hagan por favor cómplices de sus fracasos ni siquiera de sus éxitos muchas gracias